bilkura honen emaitzak aberasgarriak izatea comparezco hoy para presentarles en nombre del gobierno vasco

poder trasladarles las principales características líneas y contenidos de este plan

constituirá un instrumento fundamental en la labor del gobierno para mejorar la salud y la calidad de vida de todas las personas que convivimos en euskadi mi intervención se centrará en las siguientes cuestiones en primer lugar con el fin de enmarcar el contexto sanitario repasaré la situación actual en que nos encontramos respecto a la salud en euskadi basándome en la evaluación del anterior plan de salud

y en los datos aportados por la encuesta de salud de euskadi dos mil trece en segundo lugar apuntaré el nuevo enfoque que hemos querido dar a este plan de salud en concreto en la manera que hemos abordado la transversalidad necesaria

en salud como tercer punto haré un repaso de las principales características del plan un plan de salud en coherencia con los objetivos sociales de las políticas de este gobierno pero también para un tiempo distinto seguidamente expondré el cuerpo principal del plan las áreas prioritarias

indicadores de seguimiento y una mención especial a los colectivos preferentes de atención

los mecanismos previstos para su ejecución y seguimiento y finalizaré haciendo un repaso a la metodología breve de la elaboración del plan

el primer paso antes de iniciar la redacción del plan fue la evaluación del anterior plan de salud

las principales conclusiones a que se llegaron fueron durante el periodo del anterior plan de salud ha continuado aumentando

al nacer así en dos mil trece una niña

viviría de media ochenta y seis coma cuatro años y un niño tendría una esperanza media de vida de setenta y nueve coma cinco años paralelamente ha evolucionado también

así en dos mil trece para las mujeres era de setenta y tres coma uno años

sesenta y nueve coma tres ha continuado la reducción de la mortalidad infantil en dos mil once la tasa era de dos coma seis fallecidos

ha disminuido también la mortalidad en edades juveniles y en general por causas externas ha disminuido también la prevalencia del consumo de tabaco

al humo del mismo ha aumentado la prevalencia del consumo habitual de alcohol y también de alguna otra droga ilegal en los últimos años ha aumentado de manera considerable la obesidad así en los mayores de dieciséis años la obesidad es un veinticinco por ciento superior a la tasa del año dos mil dos de inicio del anterior plan de salud otro aspecto importante es el sedentarismo en el año dos mil trece afecta a un treinta y cuatro por ciento de las mujeres

ha continuado aumentando la prevalencia de diabetes mellitus especialmente en los mayores de sesenta y cuatro años

ha disminuido la mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio si bien

en las mujeres y la segunda en los hombres también se ha reducido la mortalidad general por cáncer

y colón en mujeres por el contrario ha aumentado la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres una relación directa con el tabaco y por cáncer de colón

continuaré aportándoles una visión rápida del estado de salud de la población de euskadi basada en datos concretos en todo caso en el documento del plan

una visión más amplia con numerosos datos y gráficos euskadi como es conocido presenta una tasa de natalidad muy baja así en el dos mil doce era un nueve coma tres por ciento lo que junto

de nuestra sociedad que continuará incrementándose a corto y medio plazo en dos mil once fecha del último censo

era de cuatrocientos treinta y uno mil cuatrocientos sesenta personas un diecinueve coma ocho por ciento

se prevé que para dos mil veinte alcance una proporción del veintidós coma cinco por ciento del total también la proporción de personas mayores de ochenta y cuatro años era en el censo del dos coma nueve por ciento

es reseñable también que vivían en el último censo en euskadi quinientos cuarenta y seis personas con cien o más años la mayoría

ha venido acompañado de un incremento de los años vividos libres de discapacidad un objetivo muy importante

el año pasado la autovaloración personal de la salud de las personas otro indicador importante y reconocido como un buen predictor

y mortalidad de la población ha mejorado en el último quinquenio en el año dos mil trece

y el setenta y nueve por ciento de las mujeres valoraba su salud como buena o muy buena los datos de la encuesta de salud del año pasado evidencian también que las personas de clase social más baja tienen una percepción de la salud peor y además esta diferencia es más marcada en las mujeres a medida que ha progresado el envejecimiento el número de pacientes crónicas y con dependencia ha aumentado en paralelo y también la complejidad y el número de sus patologías según datos del año dos mil doce

de la población vasca presenta alguna enfermedad crónica y una proporción importante de estas personas tiene dos o más enfermedades y necesita asistencia sanitaria entre las patologías con mayor prevalencia están por orden

los problemas articulares y la depresión si nos centramos en la asistencia sanitaria en el año dos mil trece vemos que

ha precisado un ingreso hospitalario uno de cada veinte una intervención quirúrgica cuatro de cada diez han sido atendidos en una urgencia de un hospital

a un médico especialista y cinco veces al médico de familia o al pediatra es un reflejo

pero también muestra la confianza que este ofrece a la población con relación a la mortalidad

ha mantenido una tendencia ascendente en la última década así de acuerdo al registro de mortalidad en el año dos mil doce

a él se deben el treinta y dos por ciento de los fallecimientos le siguen las enfermedades

cardiocirculatorio con un veintinueve por ciento de los mismos aunque este orden se invierte en las mujeres en las que la primera causa de mortalidad son las enfermedades circulatorias y la segunda el cáncer en relación a las conductas

un aspecto muy importante según la encuesta de salud ha aumentado la prevalencia de consumo habitual de alcohol

ha disminuido la prevalencia de consumo de tabaco también en ambos géneros con un descenso más marcado

fruto seguramente de la eficacia de la legislación antitabaco entre otras iniciativas los datos de la encuesta euskadi y drogas del año dos mil doce indican una disminución significativa de la prevalencia del consumo de drogas ilegales consolidándose la tendencia que se inició en el año dos mil cuatro

sigue siendo alto y presentamos una de las tasas de consumo de cannabis mayores de la unión europea azken hamar urteetan gure herrian

murriztu egin dira con respecto al gasto sanitario otro aspecto muy importante en los tiempos actuales en euskadi basándonos en datos del dos mil nueve los últimos que aparecen en la cuenta de salud del eustat el porcentaje

dedicado al gasto sanitario era de un ocho coma ocho con un gasto entonces por habitante

en el gasto sanitario total no solo está incluido el presupuesto del departamento de salud sino también aquellos presupuestos de otras administraciones

se estiman van dedicados a este fin en el año dos mil doce seguíamos dedicando al gasto sanitario cantidades similares en concreto manteníamos el mismo porcentaje de pib el ocho coma ocho y dedicábamos

euros por habitante lo que sin ninguna duda indica

el esfuerzo dedicado a la salud a pesar del complicado momento de crisis económica que atravesamos si nos fuéramos a una comparación internacional

del año dos mil once el último actualizado veríamos

se situó en la media de los países desarrollados con un nueve coma tres por ciento si solo tuviéramos en cuenta el gasto público en salud

situándose un poco por debajo de la media de los países más desarrollados dónde es del seis coma siete por ciento cuando comparamos el gasto total en salud en dólares a igualdad de precios de compra podemos apreciar que en el año dos mil once euskadi gastó

per cápita por encima de la media de españa tres mil setenta y dos per cápita y por encima de la media también

dólares per cápita nuestro gasto total en salud en dólares a igualdad de precios de compra es por ejemplo superior a países francamente desarrollados

países centrales en la unión europea como pueda ser italia o el reino unido en relación a la atención sanitaria en euskadi los datos reflejan sin complacencia que tenemos un buen sistema sanitario

hemos conseguido consolidarlo un aspecto en el que hemos alcanzado un desarrollo muy importante y me gustaría resaltar son los programas de cribado prácticas preventivas con amplia difusión y muy buena aceptación por nuestra población así resaltaría el cribado del síndrome de down y otras cromosomapatías en donde en el año dos mil doce participaron

mujeres y que presenta un rechazo por debajo del uno por ciento el cribado neonatal de metabulopatías la llamada prueba del talón ampliada como conocen este año en el dos mil doce participaron veinte mil trescientos cuarenta y ocho recién nacidos y tiene una tasa de rechazo por debajo

nuestro programa de vacunación infantil una de las intervenciones preventivas más importantes

superiores al noventa por ciento de todos los niños y niñas

y además es un calendario amplio el programa de asistencia dental infantil el padi que atendió en dos mil doce

y niñas con una cobertura del sesenta y cinco coma nueve por ciento el programa de detección precoz del cáncer de mama que en dos mil doce reflejó una participación del ochenta coma siete por ciento del total de las mujeres diana en la comunidad el programa de detección precoz

hasta completarla y presentó el año pasado una participación del sesenta y seis por ciento también me gustaría reseñar en este ámbito

y enfermedades de transmisión sexual los programas de deshabituación tabaquica y las campañas de vacunación antigripal

por lo que se refiere a los indicadores de desempeño y eficiencia del sistema señalar que en las dos últimas décadas ha incrementado notablemente su productividad la atención primaria ha llegado a todos los núcleos de población por pequeños que sean

están alrededor de los diez minutos de media por consulta y las de pediatría superan este tiempo en los hospitales en los últimos años

por ponerles un ejemplo las estancias quirúrgicas han pasado en los últimos veinte años

a los tres coma siete días del año pasado gracias fundamentalmente a la ambulatorización de procedimientos quirúrgicos a las nuevas tecnologías

y también creo al esfuerzo compartido de clínicos y gestores para hacer más eficientes los procesos asistenciales la lista de espera quirúrgica otro de los indicadores tradicionales para valorar la gestión de los servicios de salud a pesar

se mantiene dentro de estándares adecuados también es destacable el desarrollo en materia de seguridad del paciente

donde todas las organizaciones están comprometidas con una cultura de seguridad que está consiguiendo reducir

ikas dezan un aspecto muy importante es la valoración que los ciudadanos hacen de nuestro sistema sanitario la valoración global de la asistencia

fue considerada excelente muy buena o buena por más del noventa y cinco por ciento de las personas encuestadas tanto en atención primaria como en la mayoría de las prestaciones hospitalarias por no mirarnos solo

en el barómetro sanitario del dos mil doce realizado por el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad en el país vasco el ochenta y dos coma ocho por ciento de las personas opinaba que el sistema sanitario funcionaba bien o bastante bien bien después de este repaso del contexto me gustaría darles a conocer el enfoque que hemos buscado para el plan

para nuestra sociedad para este gobierno la salud tiene la consideración de derecho humano a esta idea responde el lema del plan

mediku sorospena eta gizarte zerbitzuak con estas consideraciones éticas

reflejadas también en los principios que siempre han inspirado el sistema sanitario de euskadi iniciamos en el departamento de salud la redacción de este plan conscientes al mismo tiempo del envejecimiento de nuestra población de la situación económica actual

para el futuro así el plan tiene en primer lugar la vista puesta en la necesidad de mantener y mejorar nuestro sistema sanitario como público universal y de calidad con el objetivo de seguir obteniendo buenos resultados en salud

eficacia y eficiencia pretendemos también reforzar la confianza de las personas en su sistema sanitario y hacer de las mismas

corresponsables y empoderados con su propia salud y también empoderados en la definición y organización y mejora de los servicios sanitarios porque la salud no puede ser responsabilidad exclusiva del gobierno

para el gobierno vasco constituye una prioridad el desarrollo de las políticas de salud y del sistema sanitario como pilares fundamentales de la calidad de vida y de bienestar

en euskadi es conocido la salud es el servicio público mejor valorado por los ciudadanos consideración que no es nueva contamos con un modelo sanitario construido desde el consenso político y social

eminentemente público referente en el estado y también para los países con modelos sanitarios basados en sistemas nacionales de salud

que aunque disfrutamos de unos resultados positivos en salud no hemos llegado por igual a todos los grupos sociales tenemos desigualdades sociales en salud desigualdades que se definen como aquellas diferencias injustas y evitables entre grupos que están definidos económica demográfica o geográficamente hay estudios que indican que la contribución de las desigualdades en salud a la mortalidad es superior a la de otros factores de riesgo por ello uno de los hilos conductores

es prestar especial atención a los grupos más vulnerables badago beste elementu inportante bat osasun plana eratzen dutenen artean

es un plan de gobierno no hemos presentado un plan sectorial incide en la salud y en el bienestar de todas las personas parte de una concepción

e intersectorial para la articulación de políticas y acciones entre todos los actores sectores y administraciones en euskadi

es la que consideró la mejora de la salud como un objetivo

todas las instituciones públicas cuya acción incide o puede incidir sobre la salud estamos hablando del concepto de salud en todas las políticas un concepto esencial para garantizar la equidad y la sostenibilidad del sistema sanitario porque avanzar en salud desde nuestra situación actual no es fácil y para ellos es imprescindible situar la salud como un activo

no es solo gestionar el sistema sanitario estamos convencidos de que este enfoque es una oportunidad para avanzar y generar salud desde todas las instituciones públicas

por la salud basada en la consideración de las políticas de salud como estrategia de país y una buena gobernanza de la salud basada esta sí en la gestión del sistema sanitario bajo los principios

y por supuesto la necesidad de avanzar en el enfoque de género y en cauces de participación ciudadana por todo ello este plan de salud es una de las principales iniciativas del gobierno en materia de salud

zuzendutako gure gobernu ekintzan me gustaría también resaltar el planteamiento trasversal e intersectorial

en las políticas de salud establecidas por la unión europea principios que coinciden en subrayar la necesidad y oportunidad de una perspectiva integral

del sector sanitario por recuperar la salud individual perdida sino también como el esfuerzo conjunto de todos los sectores por prevenir y promover la salud colectiva hemos pretendido hacer un plan para el presente y el futuro próximo en cohesión y coherencia con las principales estrategias internacionales con la situación y acción actual del gobierno vasco y con los planes de salud anteriores

que en su artículo trece definía al plan de salud de euskadi como el instrumento superior de planificación y programación del sistema por el que se establecerán

las prioridades que durante el tiempo de su vigencia han de ser atendidas con los recursos

el plan de salud ha sido uno de los primeros planes de gobierno aprobados esta legislatura desde su inicio las personas del departamento de salud

y constituyera uno de los objetivos prioritarios del primer año de la legislatura gure gobernu programan azaltzen zen moduan gure lehentasuna da

la sintonía y coherencia con los anteriores planes el plan de salud de mil novecientos noventa y cuatro la política de salud para euskadi dos mil y el plan de salud dos mil dos dos mil diez

está además alineado con algunas de las principales directrices de organismos internacionales de referencia en materia de salud como el marco estratégico de la comisión

la declaración de río de janeiro de la oms dos mil once y el programa de salud para el crecimiento dos mil catorce dos mil veinte del parlamento y consejo europeos y así con las personas dando sentido

con realismo en continuidad con la labor de ejecutivos anteriores el plan de salud que presentamos mira al futuro y propone estrategias y objetivos concretos

de aquí al escenario de dos mil veinte pretendemos responder de una sociedad cada vez más informada y más exigente en relación a su salud y también a la gestión de los recursos públicos para ello es imprescindible un enfoque de la salud más amplio

al propio sistema sanitario y que trabaje en prevención y promoción de la salud y en mejorar estilos de vida porque la salud debe hoy ser entendida como el resultado de inmensos factores y condicionantes asociados

familiar y social a la educación a los servicios sociales al urbanismo al transporte público al agua el aire la dieta el ejercicio físico

izaten jarraitzeko este plan está dirigido al conjunto de la sociedad vasca

con un sistema de salud de calidad reconocido socialmente y con unos niveles de salud favorables en este contexto entendemos que las oportunidades y retos que debe asumir el plan son alcanzar un compromiso interinstitucional para que la salud

como metas del conjunto de las instituciones públicas disminuir las desigualdades sociales y de género en salud

promover entornos y conductas saludables mediante proyectos desarrollados preferentemente en el ámbito local y comunitario inexcusablemente en colaboración

por un sistema sanitario público con cobertura universal y con prestaciones de calidad y seguir fortaleciendo el nivel asistencial

adaptar el sistema sanitario para afrontar con calidad y eficacia el reto del envejecimiento nuestro principal reto sanitario y sus consecuencias incremento de enfermedades crónicas y de dependencia y en línea con lo anterior

la atención socio sanitaria centrándome ya en propio documento del plan este está estructurado en varios apartados

el marco conceptual que define la salud en el contexto de nuestra sociedad

que se dan entre la salud individual de las personas y el entorno físico y social en el que viven b

inspiradores del plan que no pueden ser otros que los definidos en el año noventa y siete en la ley de ordenación sanitaria de euskadi universalidad equidad solidaridad calidad de servicio y participación ciudadana a los que en las circunstancias actuales es imprescindible añadir la sostenibilidad

que describe el actual estado de salud de la población en euskadi el papel que desempeñan los servicios sanitarios y los retos y oportunidades

las áreas prioritarias así se han detallado cinco áreas prioritarias con treinta y cinco objetivos ciento cuarenta y seis acciones

del plan e la implantación y seguimiento que detalla la estructura organizativa para el mismo y concreta las estrategias

y f los anexos que ofrecen información complementaria como es la metodología de elaboración la evaluación del plan anterior y las recomendaciones relevantes que hemos tenido en cuenta

las cinco áreas abordadas y definidas como áreas prioritarias son

las personas con enfermedad tercera el envejecimiento saludable cuarta la salud infantil y juvenil y quinta los entornos y conductas saludables no se les habrá escapado que dos de ellas

y las otras tres hacen referencia específica a colectivos concretos de personas presentaré en primer lugar

y la quinta la primera equidad y responsabilidad tiene por objeto fortalecer nuestro sistema sanitario su equidad y calidad e incorporar la salud y la equidad en salud a todas las políticas públicas

es reducir las desigualdades sociales y de género en salud en la población vasca y mejorar la situación especialmente de los colectivos más desfavorecidos se pretende en concreto alcanzar un compromiso entre todas las instituciones

como estrategia transversal de país dirigida a hacer que la salud

sean asumidas como una meta más de las políticas públicas favorecer la equidad en el sistema de salud de euskadi incluyendo su perspectiva

dar prioridad a los problemas de salud de los colectivos más afectados por la desigualdad social entendiendo como lo más adecuado para conseguirlo el potenciar la atención primaria y la atención comunitaria apoyar el desarrollo de políticas públicas que actúen sobre determinantes estructurales e intermedios que inciden en la salud

mediante políticas globales de protección social como es la educación la vivienda el transporte activo

el empleo la conciliación de la vida personal familiar y laboral la vigilancia del riesgo medioambiental la seguridad alimentaria

entre otros potenciar la participación y el empadronamiento de las personas

atendiendo también aquí a las diferencias de género y a la diversidad de colectivos y situaciones potenciar la prevención y el tratamiento de la violencia contra las mujeres

entre los sectores implicados promover y desarrollar la monitorización e investigación también sobre desigualdades en salud

e innovación como generadoras de conocimiento al servicio de la mejora de la salud y de la calidad eficacia y eficiencia de nuestro sistema

y conductas saludables se centra en la promoción de la salud y los entornos y estilos de vida saludables también como no puede ser de otra manera para tener éxito a través de la colaboración intersectorial

de la actividad física de la dieta del entorno ambiental y laboral de la salud mental de la obesidad del tabaco del alcohol de otros tóxicos etcétera aquí concretamos propuestas en materia de educación física

definidas en el plan de actividad física fortaleciendo

centros educativos y recursos municipales promocionando un urbanismo saludable etcétera también hay propuestas en materia de alimentación saludable medidas para la prevención de la obesidad propuestas para mejorar la salud sexual y reproductiva para la prevención del tabaquismo del consumo excesivo de alcohol

y también de conductas adictivas cada vez más frecuentes también para la promoción de la salud mental y emocional

más afectados por estos menores mujeres y personas mayores con medidas

de relación y participación social medidas para garantizar la calidad del entorno ambiental incidiendo

del agua el aire el suelo los alimentos y también la necesaria información ciudadana sobre estos aspectos medidas también para la prevención de riesgos en los entornos laborales como es la mejora de la vigilancias

el desarrollo de la estrategia de seguridad y salud en el trabajo etcétera así llegamos a las tres áreas dirigidas a colectivos concretos de personas personas con enfermedad las personas mayores y los niños y jóvenes

las personas con enfermedad aquí el plan presta como no podía ser de otra manera especial atención al cáncer

las infecciones comunitarias las enfermedades cardiovasculares

las enfermedades de baja prevalencia o raras los trastornos mentales las demencias y las adicciones disminuir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardíacas enfermedades célulovasculares

y la diabetes diseñar y aplicar intervenciones de abordaje de la obesidad mejorar el diagnóstico tratamiento y calidad de vida

garantizar una atención adecuada a pacientes con enfermedad mental

disminuir las infecciones de transmisión sexual y la infección

mejorar la atención a las personas con enfermedades de baja prevalencia o raras en el área tres

se ha comentado con anterioridad las perspectivas demográficas de euskadi así para las personas mayores

a promover un envejecimiento activo y la autonomía de las personas mayores priorizando el abordaje comunitario de la salud y sus determinantes sociales en el ámbito local

adecuar la atención sanitaria para abordar de forma eficaz los problemas de salud derivados del envejecimiento priorizando la recuperación

es intervenir sobre la población para disminuir la morbilidad la mortalidad y la dependencia de las enfermedades con mayor

las nuevas tecnologías en base a la evidencia de su utilidad y eficacia

en línea con las estrategias de innovación pública garantizar la continuidad de cuidados de las personas mayores en su propio domicilio o en su entorno

socio sanitaria adecuada promover un modelo de atención a las personas con cáncer y mejorar la atención a las personas y familiares con necesidad de cuidados paliativos

en relación al área cuatro salud infantil y juvenil los niños y niñas

y jóvenes son otro de los colectivos prioritarios en aras a asegurar su desarrollo óptimo y saludable el futuro de nuestra sociedad y a reforzar sus competencias respecto de su salud para que puedan adoptar decisiones seguras y saludables en esta importante etapa de la vida y las mantengan posteriormente en lo relativo a este colectivo pretendemos promover la salud infantil a través de intervenciones integrales

en el proceso de crianza favorecer la utilización del padi mejorar la oferta de asesoramiento genético vigilar el riesgo de malnutrición en coordinación

mejorar los mecanismos de prevención de la desprotección de la infancia etcétera desarrollar e implantar el modelo de atención temprana entre los servicios sociales los servicios educativos y los servicios de salud impulsar un plan para la prevención de la obesidad infantil que incluya aspectos de promoción incluyendo acuerdos con la industria alimentaria y de restauración colectiva implantada en nuestra comunidad

y la sal especialmente en la alimentación infantil promover hábitos saludables en la juventud y disminuir sus conductas de riesgo

el período de vigencia del plan es de siete años similar al del plan anterior

que hemos considerado adecuado para percibir cambios y resultados en los objetivos poblacionales de salud el año dos mil veinte es el horizonte planteado

plazo que coincide también con planes importantes definidos por otros organismos internacionales por ejemplo el acuerdo salud

europea de apoyo a la acción por la salud y el bienestar en todos los gobiernos y en la sociedad que se adoptó en dos mil doce por los cincuenta y tres países miembros

de la oms finalmente les expondré la sistemática y estructura para el seguimiento y evaluación del plan de salud un aspecto importante

vamos a hacer un seguimiento del plan en dos dimensiones la dimensión de gobierno

y aquí tendremos un novedoso nivel interdepartamental donde figurará y dirigirá la comisión directora del plan de salud

el lehendakari la principal autoridad del país y cuya finalidad es revisar y sancionar las estrategias y objetivos generales del plan de salud

de salud en todas las políticas y el enfoque de un desarrollo sostenible en paralelo y en este mismo nivel para el apoyo se pondrá en marcha un comité técnico de salud en todas las políticas

cuya finalidad será proponer y diseñar las acciones pertinentes que desarrollen las estrategias de intervención propuestas en el plan

también tendremos un nivel interinstitucional donde actuará el actual consejo de salud de euskadi una estructura ya existente y donde están representados

agentes en lo relativo a la dimensión de gobierno de la salud la gestión del sistema sanitario estará centrado en el nivel intradepartamental

el órgano de seguimiento será el consejo de dirección del departamento de salud

con un comité técnico del plan de salud que realizará una evaluación periódica

en base a los indicadores descritos y a los procedimientos métodos y herramientas que se vayan determinando el consejo de gobierno aprobó el plan el pasado veintitrés de diciembre

inmediatamente la comparecencia ante este parlamento para proceder a su presentación donde hoy esperamos recibir las aportaciones de la cámara antes de proceder a su despliegue y desarrollo quisiera subrayar también

ha sido fruto de un amplio proceso participativo con más de un centenar de profesionales y entidades diferentes bertan pazienteak

aritu dira lan eta aportazioekin también me gustaría dejar constancia de nuestro reconocimiento y agradecimiento por su labor quisiera hacer también un breve apunte sobre la perspectiva presupuestaria del plan de salud otro aspecto

el plan como se ha transmitido fija el marco estratégico y las prioridades de la política sanitaria hasta el año dos mil veinte como no puede ser de otra manera el nivel de actuación de cualquier iniciativa del gobierno quedará supeditado a las cuantías límites y mandatos

en cada ejercicio presupuestario al aprobar los presupuestos el plan tampoco puede ni debe obviar el actual contexto económico y presupuestario que en los últimos ejercicios ha obligado a reajustes

y recursos disponibles aunque es de sobra conocido que el reajuste en euskadi

ha sido bastante menor al aplicado en otros ámbitos de la administración estos aspectos han estado muy presentes al determinar la orientación del plan de salud
en este sentido cabe señalar isiltasuna mesedez

en exclusiva de los recursos económicos del departamento de salud sino también de los del resto de departamentos del gobierno y de otras instituciones

interdepartamental interinstitucional e intersectorial cuyo objetivo es mantener y mejorar el bienestar y la salud de la sociedad en conjunto

de cada una de las áreas prioritarias del plan de salud y su impacto presupuestario no se corresponde con el esquema y la estructura del presupuesto del gobierno es decir

entre las previsiones contempladas en el plan y las dotaciones presupuestarias del departamento de salud por tanto el plan asume la importancia del esfuerzo económico requerido en la confianza de que para el gobierno y el resto de instituciones implicadas

inasumible sino que su pretensión es inspirar y orientar la actuación de la iniciativa posibles es un plan estratégico

con las necesidades de las personas finalizando en el ámbito de la perspectiva de género observarán en el plan

anteriores que impulsaban la salud de las mujeres como un área prioritaria especifica

era más conveniente dar un enfoque de género al plan en su conjunto desde el ámbito de la salud podemos y debemos contribuir en gran medida a la igualdad entre mujeres y hombres y una buena forma de hacerlo todas y cada una de las políticas tengan incluida y presente la perspectiva de género así se ha considerado una estrategia

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor consejero señor lehendakari

hoy debatimos sobre uno de los aspectos que sin duda más preocupa

la salud así lo reflejan todos los estudios sociológicos y todas las encuestas la secretaria de salud y servicios humanos

destacó la salud como algo que va más allá de los consultorios médicos y las salas de operaciones resaltando la necesidad de la colaboración intersectorial

gobernanza escribió que salud es mucho más que eso es lo que comemos respiramos trabajamos y vivimos

algo de humor a la cuestión escribió que la única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres beber lo que no te gusta y hacer

hubiera conocido a este parlamentario habría añadido que sería conveniente asistir a menos comisiones e intervenir

pero de momento no va a poder ser aunque tampoco es esto seguro fernando savater escribió que aliviar

en eso consiste la verdadera salud aunque también se tosa de vez en cuando si esto fuera realmente así la salud de este parlamentario habría mejorado en estos últimos cinco años pero ciertamente dudo que esto sea así valgan estas

sobre un asunto realmente importante que debatimos hoy aquí lo cierto es que el gobierno nos plantea un plan de acción para los siete próximos años e incluye un total de treinta y cinco objetivos y ciento cuarenta y seis acciones

es un debate complejo y difícil tenemos que reconocerlo ya que es imposible entrar en todos y cada uno de esos objetivos y en cada una de esas acciones

crítica con algunas de las propuestas que se realizan de forma que estas críticas sirvan también para mejorar este plan que creo que es el objetivo de todos los grupos podemos iniciar este análisis señalando que es prácticamente imposible estar en contra o mostrarse crítico con los objetivos del plan que podríamos resumir como mejorar los resultados

bienestar y salud para las personas así como con los principios que lo inspiran universalidad solidaridad equidad calidad de los servicios de salud

no podemos estar en contra ni con estos objetivos o ni de estos objetivos ni de estos principios justo kontrakoa helburu horien eta printzipio horien alde

el plan es ambicioso no podría ser de otra manera pero es llamativo que en este momento tan complejo de crisis económica y de parón de la actividad se plantee aumentar la esperanza de vida libre de discapacidad a los setenta y dos años para los hombres

que nuestros índices actuales sin duda un objetivo ambicioso pero

de cumplir en nuestra opinión o reducir la tasa de incidencia y mortalidad del cáncer un diez por ciento o los índices de consumo de alcohol y tabaquismo o la lucha contra la obesidad o la reducción de los suicidios o actuaciones para reducir la hipertensión

ya digo que son objetivos ciertamente ambiciosos que ojalá puedan alcanzarse

todos los grupos de esta cámara y la mayoría de la sociedad perciben que disponemos en euskadi

esto hay que decirlo un sistema sanitario que se ha ido construyendo en las últimas décadas con un gran esfuerzo presupuestario y con una gran dedicación de los profesionales de la salud en esta misma línea podemos citar brevemente los resultados de la encuesta de salud de la comunidad autónoma vasca de dos mil trece un informe quinquenal que reúne las respuestas de la ciudadanía sobre sus hábitos de vida

y la percepción sobre su salud ocho de cada diez vascos creen que su salud es buena el número de personas que opina que su estado es bueno

en la última década cosa que evidentemente está muy bien unos datos muy buenos excepto en un aspecto empeora la percepción que se tiene sobre bienestar psíquico o mental es decir partimos de una buena base y tenemos que reconocer que nuestro sistema público de salud es de calidad esto es cierto aunque en euskadi estamos sufriendo

central se están aplicando en todas las políticas sociales lo cierto es que aquí también recortes ha habido reducciones presupuestarias y obviamente también los notamos y lo sufrimos de hecho ya digo que aquí también hemos sufrido recortes

en el uso de sus competencias se está reduciendo el personal de nuestros hospitales y en todo el sistema sanitario no se cubren bajas permisos o vacaciones

las plantillas están mucho más ajustadas y la presión con la que trabajan los profesionales sanitarios

sin duda esta situación tiene incidencia en los servicios públicos que se prestan y en este caso en los servicios sanitarios que se prestan por lo que la atención digamos que no es tan buena

hace algunos años ha habido ya digo recortes y reducciones presupuestarias que nos han afectado espainiako gobernuaren murrizketak eta hemengo

recorte los presupuestos dedicados a esta materia en todo el periodo de vigencia del plan e incluso que tengan un crecimiento sostenido más allá de que

y todas aquellas políticas públicas que de un modo u otro tienen incidencia en la salud de los ciudadanos en nuestra opinión

relevante y nosotros queremos que sea un éxito porque la salud de los ciudadanos vascos está en él comprometida por eso reclamaríamos un compromiso con su financiación

y a las políticas que tienen incidencia en la salud no solo sin recortes sino con incrementos anuales que por cierto compensen

en los últimos ejercicios compartimos elconcepto de salud en todas las políticas asumido por este gobierno y recomendado desde hace bastantes años

algo recogido también en otros planes anteriores de otras comunidades autónomas pero no lo vemos claro en este plan más allá de las buenas palabras o intenciones

por otros departamentos como señalaba no vamos a hacer un análisis punto por punto acción por acción o indicador por indicador pero sí vamos a cuestionar

nos parece preocupante que no se incluya un objetivo de reducción de las listas de espera dejarlo en un genérico reducción progresiva de las listas de espera quirúrgica nos parece

por cierto ya hablaríamos más adelante sobre ello quizás merezca una iniciativa parlamentaria específica pero pensamos que habría que articular un sistema verdaderamente

no solo de información sino de elaboración de estas listas de espera para que pudiéramos conocer el tiempo real de espera para poder ser atendido en euskadi creo que aquí también

como digo más adelante plantearemos alguna iniciativa concreta sobre la cuestión respecto al objetivo de investigación e innovación nos parece que es poco ambicioso

indexadas no nos parece razonable ni tampoco demasiado ambicioso creemos que se debería haber incluido objetivos tangibles en este campo de la investigación más allá de las publicaciones el capítulo más amplio es el área prioritaria dos a las personas con enfermedad y su primer objetivo se refiere a la atención socio sanitaria este es un aspecto fundamental que va a ir adquiriendo cada vez más importancia en los próximos años

y el envejecimiento de nuevo tenemos que criticar que da la impresión de que el gobierno no se cree mucho la integración que debe presidir la atención socio sanitaria es algo que se ve y constata a lo largo de los años y que no se acaba de cerrar

coordinar con las diputaciones y los ayuntamientos que tienen buena parte de las competencias en estas áreas y no sea tan fácil llegar a políticas comunes y conjuntas

en definitiva beneficioso para los ciudadanos y este capítulo tiene o al menos tendría que tener una relación directa con el campo de la cronicidad y este no lo pone suficientemente en valor en nuestra opinión nos parece muy bien que se hable y se incluya el envejecimiento activo la atención domiciliaria o las nuevas tecnologías pero en nuestra opinión se quedan cortos no hay una estrategia de trabajo conjunta con los servicios sociales

a la tercera edad seguimos sin tener geriatras en la mayoría de los hospitales vascos seguimos sin tener una conexión entre las organizaciones sanitarias integradas

por lo que respecta al cáncer según los datos de la estrategia de cáncer del sistema nacional de salud euskadi se sitúa entre las comunidades autónomas con mayores tasas de incidencia y de mortalidad

esófago entre otros partiendo de estos datos y de la base de que varios objetivos de reducción de cánceres y mortalidad en el anterior plan no se consiguieron cumplir y además representan una evolución incluso negativa nos gustaría saber por qué

del diez por ciento y no digamos que otra cifra es decir en qué se para dar ese dato y no otro qué es lo que sustenta a ese dato consideramos que sería conveniente que en el país vasco se desarrollara una estrategia específica en cáncer

y de la unión europea y que debería coordinarse con este plan de salud que hoy debatimos

y queremos plantear una serie de cuestiones que nos han preocupado

a cumplir para el año dos mil veinte las enfermedades raras son prácticamente inexistentes para este plan lo mismo podemos decir para la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica nada vemos relacionado con la política de trasplantes y lo mismo podemos decir de las enfermedades degenerativas neurodegenerativas o musculares aunque incluyen un área prioritaria de salud infantil y juvenil nos extraña que no se haya incluido ni una sola referencia a los cánceres infantiles

y objetivos concretos tampoco vemos ninguna referencia al calendario de vacunación tal vez porque ese considera que es perfecto y no hay nada que cambiar ni revisar en él vemos también que se constata que somos una de las regiones europeas con mayor consumo de cannabis

como duras especialmente la cocaína y las drogas sintéticas

sociedad incidencia que se traduce en infinidad de efectos perniciosos de todo orden como todos perfectamente sabemos y nos sorprende

el del consumo de las drogas duras nos parece insuficiente y poco ambicioso el área dedicado a la investigación y a la innovación

y sus líneas de trabajo para el futuro donde deberíamos encontrarnos con biocruces y por qué no en un futuro cercano

del hospital universitario de álava queremos lanzar también una propuesta porque vemos una gran laguna en este plan de salud

que podríamos denominar salud y medio ambiente según la organización mundial de la salud alrededor de una cuarta parte del conjunto de las enfermedades para la población general

otros datos aportados en la estrategia europea de medioambiente y salud estiman que los factores ambientales suponen el veinte por ciento de la incidencia total de enfermedades por otro lado

eurobarómetro su preocupación por las repercusiones potenciales del medio ambiente sobre su salud por ello propondríamos que se introdujera un apartado

se pudieran identificar estos riesgos medioambientales para la salud y sus acciones para minimizarlos así como los indicadores a conseguir en el espacio

hau inportantea irudituko litzaidake se trataría de identificar los factores de riesgo ambiental que ocasionan alteraciones en la salud con especial énfasis en cáncer en enfermedades respiratorias y alteraciones endocrinas y del desarrollo

de analizar los factores de riesgo y proponer para cada factor de riesgo identificado y analizado el conjunto de medidas más adecuado para minimizar su impacto

de fomentar la investigación básica clínica y epidemiológica en relación con la contaminación ambiental nuestra última crítica y aunque es un tema menor desde el punto de vista de la salud que por otro lado estamos seguros que el señor isasi compartiría

que es solo en euskera osasuna pertsonen eskubidea guztion ardura creo que es un nuevo exceso del gobierno vasco que tampoco tiene digamos que ningún sentido tiene importancia relativa pero no

nada positivo en incluir el lema únicamente en euskera les pedimos que incluyan también el lema en castellano si no les parece mal en las próximas publicaciones ya digo que el señor isasi

por otro lado vamos a solicitar que el plan contenga una evaluación ante este parlamento el último capítulo del mismo es la implantación y seguimiento donde vemos que se crean dos comités técnicos uno en el área

las funciones del primer comité técnico serían entre otras evaluar los resultados en salud del plan de salud y elaborar el informe anual de resultados que será elevado a la comisión directora del plan de salud mientras que las funciones del segundo comité técnico entre otras realizar una evaluación periódica del plan de salud y realizar la evaluación de los indicadores establecidos en los contratos programa querríamos que periódicamente el departamento de salud el gobierno nos informe de cómo se va consiguiendo introducir o desarrollar las acciones recomendadas en el plan

propuestas consideramos que el plan tiene un desarrollo temporal o suficientemente amplio como para que periódicamente nos detengamos a analizar cómo va cumpliéndose

en qué áreas es necesario reforzar o incluso reformular los objetivos

para el propio plan y para su éxito es decir queremos que se traigan a la cámara esos informes elaborados por el comité técnico de salud en todas las políticas

del plan de salud en resumen y para ir terminando nos parece que el departamento el gobierno ha hecho un esfuerzo notable en la elaboración de este nuevo plan de salud lo reconocemos sin ningún tipo de problema

combatir las desigualdades y prestar una atención especial a los grupos más vulnerables

un buen principio si somos capaces de implementarlo en todos los estratos del sistema sanitario y del resto de áreas con incidencia en la salud desde la alimentación hasta el medio ambiente pasando por los entornos laborales y cotidianos

por lo tanto nuestras aportaciones y nuestras propuestas de resolución van a ir encaminadas en todo momento a intentar fortalecer y mejorar el plan que es lo mismo que decir que queremos fortalecer nuestro sistema de salud universal público y de calidad

se enfrentan a un gran reto todos nos enfrentamos a un gran reto avanzar en la prevención

mejorar la salud de los ciudadanos que sufren algún tipo de enfermedad

todo ello con una perspectiva de combatir las desigualdades existentes nos parecen objetivos que todos compartimos y que deberían alcanzarse para la cual no deberíamos escatimar ningún tipo de esfuerzo

coincidimos discrepamos en algunas cuestiones prácticas o en visiones particulares que hemos querido poner de manifiesto
en fin upyd estará siempre apoyando una sanidad pública de calidad equitativa y universal nada más y gracias eskerrik asko

legebiltzarkideok egun on guztioi todos yo creo que somos conscientes de la importancia de la salud de nuestra salud y más en concreto de la importancia de la salud cuando no la tenemos porque nos acordamos

nos sentimos mal cuando enfermamos es cuando vemos la importancia como decía de la salud y el valor de la salud y en ese sentido es la principal preocupación de los

en la salud y en tener una buena salud efectivamente tenemos un buen sistema de salud gracias a los esfuerzos realizados de los sucesivos gobiernos de los ciudadanos vascos de los profesionales pero hay que recordar que si bien en los primeros momentos fuimos pioneros en la implantación de muchos servicios técnicas y prestaciones hoy hay que decir también que esas diferencias han desaparecido y prácticamente

equiparación si no total pero a una equiparación a una homogenización en los distintos sistemas de salud entre las diferentes comunidades autónomas y precisamente porque yo creo que

en principios como la cohesión la solidaridad y la equidad

de salud independientemente de que las competencias correspondientes estén transferidas

de un plan de salud se pueden resumir a nuestro juicio en dos la consideración del valor de la salud como transversal que atraviesa todos los ámbitos y parcelas de la vida y el fomento de una cultura de la salud en donde predominen valores éticos humanitarios solidarios de equidad y de calidad

mejora y potenciación de la atención primaria necesidad de ampliar el escenario participativo

y el fomento de políticas preventivas frente a las asistenciales

una valoración positiva de las nuevas tecnologías pero sin olvidar la importancia de la relación del personal médico con sus pacientes en relación

desde el partido popular queremos plantear lo siguiente y hacer una consideración previa si bien compartimos el espíritu

nos ha parecido un tanto genérico quizás algo innato a un plan de estas

y con un periodo de vigencia tan amplio pero sí entendemos a la vez que es susceptible de ser mejorado en algunos aspectos concretos que son los que de alguna forma

cuestiones susceptibles además de ser mejoradas en un escenario en donde en euskadi y en materia sanitaria todos sabemos que se han hecho ajustes y se han realizado ajustes que también han repercutido en la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos vascos hemos visto cómo hay problemas

específicas sobre estas cuestiones la saturación de determinados servicios en determinados momentos por lo tanto sí hay que decir que estamos en un escenario de crisis económica en que más que nunca

sostenibilidad del sistema buscando fórmulas eficientes

recortes y ajustes una de las cuestiones fundamentales y a la que hace referencia el plan de salud es la equidad

la idea de un trato igualitario tiene que ir vinculada a la accesibilidad

dirigidas a mejorar la accesibilidad al sistema de colectivos con especiales dificultades creemos que hay que incidir en colectivos

al alcohol y otras drogas en especial los jóvenes y los menores

reforzar todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria en el ámbito rural especialmente con las personas mayores y en ese sentido seguir avanzando en que estas personas tengan una mayor accesibilidad a diferentes servicios asistenciales

dentro de estos colectivos vulnerables hacer hincapié a las personas que pueden tener una especial sensibilidad

o personas que pueden tener una predisposición especial en el apartado de la participación y empoderamiento

con el objeto de reforzar este punto y mejoras vinculadas a la idea clave para nosotros de dotar al ciudadano de un mayor protagonismo en la toma de decisiones para la mejora

ideas como la necesidad de concienciar a los pacientes de su propia enfermedad e implicación en su tratamiento y la responsabilidad en los cuidados la posibilidad de potenciar el autocuidado incluso la posibilidad de impulsar un foro de asociaciones de enfermos familiares y cuidadores con el fin de recabar su opinión incidiendo en el ámbito de los profesionales sanitarios también nos parece conveniente introducir la idea

y un mayor amparo a las decisiones médicas en definitiva

referencia la corresponsabilidad la salud incumbe a toda la población y potenciar la información relativa a la salud

recursos sanitarios para nosotros es una cuestión esencial en el apartado

de fármacos consideramos

buscar un mayor protagonismo de todos los agentes que interactúan en el ámbito de la salud por ejemplo en el acceso a la historia clínica del paciente

debidas y que hay que cumplir otra de las cuestiones que consideramos relevantes y en las que hemos visto también un déficit y hemos visto

es en la posibilidad de diseñar programas de detección de diabetes o de hipertensión en pacientes no crónicos

desde el ámbito de las farmacias de los agentes de farmacia y un aspecto que también consideremos oportuno que se podría abordar es la entrega del test de detección precoz del cáncer de colón al paciente y su devolución en las propias de farmacia creemos que es un elemento que facilitaría la gestión en este aspecto la mejor promoción de la salud es la prevención

es destacable el papel del farmacéutico y del personal de los servicios de atención primaria y su adecuada formación los sectores que creemos

específicas son los menores adolescentes y personas mayores

si mientras desciende claramente la tasa de mortalidad aumenta la incidencia del cáncer en algunos

y es una cuestión a nuestro juicio relevante y una conclusión importante que las políticas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento son adecuadas las hacemos bien pero sin duda existe una necesidad de reforzar todas las políticas que tiene que ver con el ámbito preventivo en cuanto a patologías concretas sí creemos también que se pueden introducir algunas cuestiones

en patologías concretas respecto al cáncer consideramos oportuno desarrollar fórmulas que mejoren la atención y proporcionen un tratamiento multidisciplinar y preferente a los enfermos con cáncer incorporando las técnicas más avanzadas creemos

en relación al cáncer y creemos que es una cuestión importante y para nosotros también es una reivindicación relevante y que siempre la hemos

que dado que se hace una referencia en el plan de salud al programa de detección precoz de cáncer de mama sí

prevención de cáncer de mama a los cuarenta y cinco años en la línea

autónomas en relación a enfermedades cardiovasculares

y cuestiones que se pueden mejorar como es la posibilidad de desarrollar programas de prevención cardiovascular con carácter multidisciplinar porque en este apartado concreto de las enfermedades cardiovasculares

y creemos que hay que hacer prevención con los enfermos cardiovasculares de carácter multidisciplinar

para este tipo de enfermos me estoy refiriendo a cuestiones concretas como control de adicciones alimentación control de estrés sedentarismo

creemos que es importante recoger la idea de la implantación de programas de seguimiento de la rehabilitación cardiovascular al inicio de la fase tres de mantenimiento la fase del alta hospitalaria de los enfermos que van a tener que hacer rehabilitación de por vida y sobre todo teniendo en cuenta

en personas jóvenes y que por lo tanto la rehabilitación va a ser un proceso muy importante

siguiendo con la prevención hemos reforzado también todo lo referente a los programas para frenar la obesidad especialmente la infantil teniendo en cuenta

dos mil dos respecto a otras enfermedades relevantes

oportuno que se recoja una mención a la realización de programas específicos en relación a las enfermedades degenerativas neurodegenerativas también

raras y sus familias también una iniciativa

y confeccionar guías clínicas concretas para su difusión entre el personal sanitario

campo de la salud mental creemos que es importante priorizar la atención en los trastornos mentales severos con especial atención a la población

y tercera edad en relación también

protocolarizar medidas para la prevención del suicidio a nivel comunitario en la atención urgente y ambulatoria de personas con diagnóstico de enfermedad mental y o factores de riesgo en relación a la cronicidad y teniendo en cuenta que el treinta y ocho por ciento de la población vasca es mayor de

teniendo en cuenta que el ochenta por ciento de las consultas de atención primaria van dirigidas a enfermos crónicos teniendo en cuenta que el sesenta por ciento de los ingresos hospitalarios

y teniendo en cuenta el envejecimiento de la población que está experimentando la comunidad autónoma del país vasco y está dando lugar sin duda a un aumento de las enfermedades crónicas y la aparición de pluripatologías y patologías más complejas creemos que este aspecto concreto y este apartado concreto se puede reforzar planteamos consideraciones en el siguiente sentido fomentar la participación activa del paciente mayor dependiente y su familia

subagudos y atender a sus necesidades específicas dar una continuidad de cuidados asistenciales a los enfermos crónicos y una atención multidisciplinar

porque así se pueden evitar muchos de los ingresos de estos enfermos

oportuno también incorporar algunas ideas concretas en relación a este apartado

en el desarrollo de proyectos de investigación en los ámbitos de actuación definidos ya en este plan de salud dos mil trece dos mil veinte sí consideramos importante que se siga promoviendo la investigación clínica de aplicación inmediata que incida directamente en la gestión y en la mejora del sistema

sí que se fomenten los sistemas orientados hacia la excelencia y la cultura de la innovación en los

y sí que consideramos importante que se impulsen todas las actuaciones que también tienen que ver con la genética así como fomentar la colaboración público privada con los agentes sanitarios por el desarrollo de programas de investigación y finalmente voy a hacer referencia a dos cuestiones que nos parecen importantes una es la relativa

la modificación de dos títulos correspondientes a dos apartados de este plan

denominado entorno sería más recomendable desde nuestro punto de vista denominarlo salud y medio ambiente también creemos que

recomendable modificarlo por el título salud y seguridad laboral

apartados específicos en relación a la evaluación del plan de salud dos mil trece dos mil veinte creemos que la evaluaciónde un plan de salud debe de ser un proceso continuo de

al cumplirse su período de vigencia y que la evaluación de todo plan constituye un aspecto fundamental dentro del proceso de planificación puesto que permitan analizar y comparar los objetivos propuestos con los objetivos

conocer las ganancias en salud obtenidas y por lo tanto consideramos conveniente realizar una evaluación periódica del mismo sin esperar

y se remita al parlamento vasco en relación al cumplimiento de los objetivos y acciones previstas en el plan en relación al plan de salud dos mil dos dos mil diez se realizaron tres evaluaciones para las cuales a nuestro juicio son escasas dos durante el mandato del señor inclán que fueron presentadas en este parlamento y una durante el mandato

pues sería conveniente también tener una evaluación más periódica del mismo para hacer como decía un seguimiento más exhaustivo

y por otra parte en cuanto a la financiación del plan al ser el instrumento en el que se marca la política de salud y no solo la política sanitaria

es vital para poder evaluar el compromiso real de la administración en este caso del gobierno vasco que el gobierno vasco adquiere con la ciudadanía vasca con el objeto de mejorar la calidad de vida en ese sentido también instamos al departamento a establecer las consignaciones económicas para la consecución de los objetivos previstos estas son las aportaciones sin duda de forma muy resumida que realizamos al plan

y compartimos algunas de las líneas o las líneas fundamentales de este plan de salud para el periodo dos mil trece dos mil veinte pero sí que

hay muchos aspectos que son susceptibles de ser reforzados mejorados y en esa línea obviamente con un ánimo absolutamente constructivo hemos planteado este debate y estas propuestas

lehendakari jauna sailburu jauna legebiltzarkideok egun on denoi hoy los socialistas analizamos este plan de salud

creemos que cumple el objetivo que se espera del plan es decir definir las líneas estratégicas de actuación a medio plazo también valoramos que lo hace acorde a lo que esperan los ciudadanos en esta segunda década

garantía de atención a todos con independencia de raza

ideología y situación administrativa y económica consideramos también que el sistema sanitario y así se recoge en el plan no está solo para curar ni siquiera tan solo para prevenir sino que es un elemento fundamental de cohesión social para disminuir las desigualdades sociales

esta idea que como digo ilumina el plan estos criterios quedaron fijados ya en el diseño del plan

documento corresponde básicamente o una parte muy importante

es decir que los conceptos básicos que los socialistas tenemos sobre salud están asumidos por este gobierno y recogidos en este plan y porque además y es lo más importante creemos que es lo que los ciudadanos esperan y lo que este parlamento viene defendiendo de forma mayoritaria porque el plan que debatimos contempla un sistema sanitario justo

asume la sostenibilidad del sistema público sin cuestionarlo por razones presupuestarias y defendiéndolo más bien desde principios de eficiencia

no mediante la exclusión de personas equidad y sostenibilidad como nos ha recordado el consejero son los ejes de este plan y deben ser los ejes de todas las decisiones que el gobierno y el parlamento deben asumir y el gobierno ejecutar

tiene los objetivos fijados hasta el dos mil veinte por tanto como digo afectará a ambos gobiernos y por eso este plan de siete años

el escenario económico pero no para hablar de carencia de recursos y justificar recortes como vemos que está sucediendo en nuestro entorno

de los recursos disponibles que estos aunque son como sabemos en este momento más justos que en otros momentos pero que sirvan estos recursos disponibles

no solo eso se concibe la salud en sí misma como un factor macroeconómico porque la salud es un derecho pero su ausencia

repercute en los sistemas asistenciales generando más demandas y detrayendo otros recursos es algo fácil de entender por ello

comunidades de nuestro entorno limitar el derecho a la salud el propio tribunal constitucional

la atención a inmigrantes en situación administrativa irregular situaba la clave del sistema sanitario público en este punto

alejados de nuestra filosofía sanitaria como es estados unidos se ha dado cuenta ha visto que siendo uno de los países del primer mundo yo diría que el primer

y esa desprotección del derecho a la salud y es el gran avance que ha realizado estados unidos se ha dado cuenta que no solo afecta a la salud general sino también

ha mirado también a euskadi para aprender hacer más gastando menos

que el acceso de todos y cada uno de los miembros de la sociedad a la atención sanitaria a parte de su concepto como derecho es un factor más de competitividad

esta intervención no pretende ser un panegírico ni sobre nuestro sistema

bastante que mejorar ni sobre este plan que admitirá correcciones que vamos a plantear más tarde ni de este gobierno con quien continuaremos discutiendo a lo largo de toda la legislatura pero nos parece fundamental qué tenemos como lo ha definido el consejero es un buen sistema sanitario construido a lo largo de treinta y uno años con el consenso político y social

qué tenemos para no perderlo tenemos que saber qué hemos construido para que nadie sienta la tentación de destruirlo

para que nadie quede al margen del camino para ello como hemos dicho

los estudios e informes de las organizaciones más prestigiosas en el ámbito sanitario así como tres elementos de análisis propios para dibujar estas estrategias

el documento del ministerio de sanidad del dos mil diez denominado avanzando hacia la equidad propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades

encuesta de pobreza y desigualdad de sociales el documento también

cien propuestas para avanzar en el bienestar y el buen trato a las personas que envejecen y la estrategia

para afrontar el reto de la cronicidad diseñada por el equipo del consejero bengoa

del anterior plan y las estadísticas demográficas son las que han permitido detectar los problemas que hoy tiene euskadi en materia de salud que avanzamos hacia una sociedad envejecida que las personas mayores tienen enfermedades crónicas y dependencia y que esa salud es peor cuando se dispone de menores recursos y las pensiones van menguando no es nuestro único problema pero sí el principal reto

blindar la actuación conjunta de las instituciones coordinar los servicios sociales y los sanitarios e intentar impedir la enfermedad con la disposición activa de los ciudadanos y creando entornos saludables en este objetivo vemos alguna de las carencias de este plan porque se propone

a los que se quiere relacionar con la salud y nos llama la atención determinadas ausencias de alguno de los planes que ya ha sido refrendado por esta cámara hace unas semanas como es el de vivienda y su impacto en la salud como ha recogido el señor consejero en su intervención

para impedirla o en su caso para facilitar la autonomía de pacientes en el desarrollo de su vida diaria pensamos que esta carencia obedece a que el gobierno como ya hemos reprochado no cree en el derecho a la vivienda

o la suficiencia energética de los hogares lo hemos visto de forma reiterada con la oposición del gobierno a las propuestas que en estos aspectos hemos señalado

la regulación del derecho a disponer de un lugar donde alojarse se entienda también que afecta a la salud repito como ha recogido el consejero en su intervención como esperamos

o que no pueden afrontar sus facturas de luz o de gas y que eso afecta también a la salud

que este plan recoge como es el plan de comercio minorista o el de euskera como actuaciones con incidencia en la salud pero que olvide la vivienda

en todo caso bastante serio sobre todo como décimos en una propuesta como es este plan de salud impregnado en el afán de acabar con las desigualdades

en este plan porque de esas actuaciones en materia de vivienda

o de detección de insuficiencias nutricionales entre los escolares también va a depender que los objetivos del plan se puedan cumplir en este sentido también creemos que el gobierno debe de establecer los peldaños a

debe fijar las estaciones intermedias debe ponerse deberes propios objetivos de actuación en esta legislatura es decir objetivos dos mil dieciséis porque este plan le compromete también a este gobierno y al que le suceda y por tanto este gobierno debe dejar claro qué es lo que él va hacer y qué es lo que deja para el siguiente

los objetivos para el dos mil dieciséis en cuanto a paro juvenil tasa de pobreza o abandono escolar como consideramos que la tasa de población sin hogar debe de situarse en el cero por ciento porque ese es el objetivo de la ley de vivienda en tramitación

respecto a la escuela de pacientes que debe de ser un instrumento esencial

para saber atender las necesidades propias pero también para inculcar el sentido de la corresponsabilidad a los pacientes y usuarios de la sanidad en general sobre el uso de los servicios públicos o establecerse metas en la formación de los profesionales al margen de las que ahora puedan recibir a través de programas financiados

y concretar actuaciones de cribado de índice de masa corporal en atención primaria

que como bien ha señalado el consejero es un problema serio

se van ampliando y cuya presentación como proceso y como riesgo para la salud es cada vez mayor también debe fijarse objetivos de atención psicogeriátrica de implantación de guías sobre dolor crónico formación de familiares cuidadores

programas de detección temprana de enfermedades raras todas estas cuestiones están incluidas en el plan pero les falta la concreción el detalle no sabemos si es porque no se atreve a comprometerse o porque realmente no tienen una idea muy clara de cómo actuar para llevar a la práctica

también creemos que debe de ser un poco más ambicioso en determinados retos como alcanzar por ejemplo el cien por ciento de la atención a los enfermos de cáncer revisiones o el de atender al cien por ciento los pacientes con necesidades de rehabilitación y me detengo un momento en este punto porque creo que es una de las tareas pendientes de la administración sanitaria y que desde luego no consideramos que sea reprochable

es una carencia que responde a las nuevas necesidades sanitarias consecuencia del envejecimiento y de la cronicidad entre otras cuestiones porque como hemos señalado antes

y evitar enfermedades pero toca también alcanzar la rehabilitación de quienes han padecido o padecen determinadas enfermedades que requieren tratamiento de rehabilitación

prolongado por sufrir una enfermedad crónica

una enfermedad reumática u otras crónicas son derivados a los servicios de rehabilitación y los profesionales son excelentes pero los recursos son claramente insuficientes

en muchos casos con afección psicológica porque las limitaciones físicas son prolongadas solo quienes disponen de recursos económicos

pueden recibir la rehabilitación adecuada el propio plan de salud reconoce la necesidad de abordar esta situación de forma estratégica creemos que al hacerlo

pero a la larga supondrá un menor gasto público porque se conseguirá mayor autonomía del paciente y menor necesidad de asistencias socio sanitaria por eso

cuente con la infraestructura pública necesaria para ello estas carencias

corregirlas mediante las propuestas de resolución pero ahora queremos quedarnos con lo que nos parece esencial en un debate monográfico para la salud en este año dos mil catorce porque ante el mismo análisis ante las nuevas necesidades de salud ante los retos del envejecimiento y la cronicidad

por qué porque estos retos generan gasto y entonces deciden excluir a parte de la población mediante el castigo económico se excluye a quienes no pueden pagar sus medicinas se excluye a quienes reciben tratamientos por cáncer u otras enfermedades

se excluye a quienes no han tenido la oportunidad de regularizar su situación administrativa y nosotros en euskadi nos hemos propuesto lo contrario por convicción y porque la exclusión además de injusticia que rompe los principios del sistema

la exclusión hace que el sistema deje de estar vigilante sobre la salud de la población y que enfermedades curables con un simple tratamiento en el domicilio acaben derivados

a través de urgencias la exclusión hace que se generen enfermedades que son evitables mediante la prevención y lo que nos proponemos hoy es pues renovar

que siga siendo un sistema eficiente en gasto sanitario

con las políticas sociales para mejorar la asistencia y con una reordenación progresiva del sistema a través de una estrategia como es la de crónicos

los socialistas planteamos este debate como una renovación y adaptación de este compromiso a través de la guía de actuación que nos ofrece el plan de salud

porque entendemos que la brutal crisis que padecemos tiene como principal víctima los derechos sociales de los ciudadanos y como principal ganador la desigualdad

organismos de izquierda revolucionaria nos lo dice también intermon oxfam y más recientemente cáritas por mucho que esto le agüe la fiesta al señor montoro y cada cual aquí podemos tener nuestra receta

pero lo que tenemos que seguir compartiendo en este parlamento es que las desigualdades patentes en tantos ámbitos

y debemos seguir garantizando los principios de equidad justicia y calidad del sistema público estos principios los consideramos que están recogidos en el plan

corresponderá desarrollarlos porque este gobierno

sabemos que le costó entender que nadie podía debía quedar sin medicamentos por falta de recursos sabemos que le costó asumir que era necesario seguir con diseños de infraestructuras sanitarias

en realidad no sabemos bien si lo ha entendido pero por lo menos lo ha asumido y sabemos que la mayoría parlamentaria está empeñada en continuar en este sentido y ahora asumiremos la tarea de proponer acciones concretas que vayan desarrollando el plan para lograr los objetivos que en él se fijan

dira betetako helburuen inguruan etengabeko ebaluazioa egiteko erantzukizuna egongo da por lo tanto en nuestra opinión este plan de salud va a servir para fortalecer el sistema sanitario público vasco busca reforzar los aspectos relativos a la equidad y la calidad del mismo se marcan como objetivo la prevención y la promoción de la salud junto a la promoción de entornos y estilos de vida saludables asimismo busca evitar desigualdades

en especial la de aquellos colectivos más vulnerables es decir las personas mayores la infancia y juventud y las personas con enfermedades crónicas sin embargo como decíamos antes todas estas ideas principales no son simplemente una lista de buenas intenciones de hecho se concretan en un número de objetivos específicos y acciones concretas orientadas a lograr resultados en salud

acciones específicas al efecto bestalde

que lo que se limita al sistema sanitario compartimos la idea expresada por el consejero

en la línea de lo que se está haciendo en los países y sociedades más avanzadas

sí pero además es necesario profundizar en otros factores como contar con ciudades y entornos adecuados trabajo en condiciones de seguridad de higiene

saludables de vida una buena calidad del aire del agua y el entorno

equipamientos deportivos que faciliten una vida menos sedentaria etcétera etcétera horregatik guztiagatik gure taldeak

lan horretan por lo tanto me gustaría terminar la intervención reafirmando que el compromiso

y el sistema sanitario público vasco es firme este plan de salud es prueba de ello y por eso lo apoyaremos porque durante el tiempo que llevamos de legislatura este gobierno vasco no ha cesado en su empeño y en adoptar

además de aprobar el plan vasco de salud en el plazo comprometido en el plazo de un año ha regulado la asistencia sanitaria para las personas inmigrantes garantizando la universalidad en el acceso a nuestro sistema sanitario

y eso lo han hecho por iniciativa propia porque creemos en la universalidad como principio inspirador de nuestro sistema de protección del derecho a la salud además ha preservado el derecho al acceso a lo tratamientos de fertilidad de las mujeres sin pareja

adolescentes de catorce a dieciséis años que precisen un ingreso hospitalario no tengan

al mismo tiempo ha mejorado la accesibilidad y proximidad de la asistencia sanitaria en todo el país con la apertura

la receta electrónica se ha desplegado definitivamente en todo el territorio el nuevo servicio personalizado de cita previa está implantado en toda euskadi la espera media para intervenciones quirúrgicas y consultas en osakidetza ha mejorado

y se ha creado por primera vez una dirección específica dentro del departamento de salud y se ha destinado más de uno millón de euros a ayudas a proyectos y a becas y a ayudas para la formación de profesionales sanitarios

escuela de salud para el empoderamiento de pacientes y la mejora del autocuidado en enfermedades crónicas pero también ha cumplido el compromiso de modificar las retribuciones de los directivos de osakidetza

y alineando sus retribuciones con las del resto de altos cargos de la administración pública vasca

a la colaboración institucional entre vecinos a pesar de tener que aplicar por imperativo legal el copago farmacéutico en euskadi lo ha hecho de la forma menos lesiva posible para nuestros ciudadanos sin que tengan que adelantar dinero por sus medicamentos

por falta de recursos económicos se ha aprobado una serie de ayudas económicas para ello beraz gure taldeak